inpartzialtasuna arbitrarietatea doble vara de medir

esta vez por parte de la presidenta de esta cámara

egiten denean cómo vamos a instar a una tercera instancia

sujeta a decisiones arbitrarias de la presidenta

zer zen inprobisazioa esan zion a mí no me importa que improvisen

traducción y dos copias hori da guardia zibilak esan ziona

y básicamente es porque hace cuarenta años se hicieron las cosas tal y como se hicieron se acostaron franquistas y se levantaron demócratas una transición dirigida básicamente por los poderes del régimen anterior

al día siguiente se convertían en padres de la constitución y ya se sabe de esos padres esta criatura

de esos polvos esta criatura de esos polvos esta criatura eta hori da

daukaguna la censura no es solo parte de un país antidemocrático está sirviendo para apuntalar un régimen cada vez menos democrático y para apuntalar para perfeccionar ese sistema es preciso leyes como la ley mordaza ley

y se dirige principalmente a reprimir movimientos populares a controlar a la población que por motivos

no comparte el estado actual de las cosas y acogiéndose a su derecho de reunión y manifestación quiere mostrar su disidencia

taldearen abesti bat debekatu duela ovni objeto verde nada inteligente

eskerrik asko mahiburu andrea la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos

por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia

para el conjunto de las personas que conforman una sociedad es así

eminente en los textos constitucionales de todos los países de nuestro entorno también en los pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos

el artículo diecinueve del pacto internacional de los derechos civiles y políticos así como el artículo diez de la convención europea de derechos humanos

con sanciones proporcionadas y sin que ningún momento estas restrinjan el debate público

de la ciudadanía tal es así que la constitución española establece límites en torno al derecho al honor a la intimidad la propia imagen

en el propio artículo diez punto dos y se emplaza en aras a la protección de la seguridad nacional de la salud o de la prevención de crímenes entre otras

se indica que toda apología del odio nacional racial o religioso

la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley la jurisprudencia constitucional indica además en nuestro en el estado español que en caso de conflicto

de expresión sino se ejerce con la intención de insultar

responde a un hecho veraz de interés público o de manera especial si esta se ejerce desde un medio de comunicación pese a esto en los últimos años estamos asistiendo a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental

recogido en el artículo veinte de la constitución española y que va más allá de estos límites cada día son más y más los casos que se suman a la lista de vulneraciones del derecho a la libertad de expresión por ejemplo

fue condenado por el tribunal supremo a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas

y amenazas a jorge campos portavoz de vox en baleares todo eso por el contenido de las letras de sus canciones y antes de entrar en prisión

su defensa asegura que en europa se pueden garantizar sus derechos y así se ha demostrado la justicia belga decidió este septiembre no extraditarlo al considerar que en su caso

de expresión también

por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones del estado por mensajes en twitter y una canción colgada en youtube a la condena de prisión se le sumaba una multa

euros el colectivo de raperos la insurgencia fueron citados a declarar en la audiencia nacional ante la magistrada carmen lamela en noviembre del dos mil dieciséis acusados de enaltecimiento de organizaciones terroristas

en diciembre de dos mil diecisiete fueron condenados por este delito a dos años y un día a causa de este día extra de condena el ingreso en prisión de sus doce integrantes es obligatorio a pesar de no tener antecedentes

sin fianza a principios de febrero de dos mil dieciséis después de representar la obra la bruja y don cristóbal

estaban acusados como ya saben todos ustedes de enaltecimiento del terrorismo

que decía gora alka eta un juego de palabras

la denuncia la presentó la guardia civil cuando la chica cumplió dieciocho años después de encontrar

de la operación araña pensada para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales

y a seis años y medio de inhabilitación absoluta por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas

la misma operación policial que detuvo a casandra y a cesar strawberry también actuó contra setenta y cuatro tuiteros

entre dos mil catorce y dos mil dieciséis algunos de los detenidos eran menores de edad

amnistía internacional citó esta operación entre los casos de restricciones injustificadas de la libertad de información expresión y reunión en su informe anual

tendrán que ir a juicio por un artículo en el que se bromeaba sobre la policía desplegada en cataluña el uno de octubre el cantante de la polla records evaristo páramos fue identificado y denunciado por la guardia civil después de un concierto

los agentes le denunciaron por haber insultado a la policía al acabar la actuación los insultos denunciados formaban parte de la letra de una jota que el cantante a menudo interpreta a capela al final de sus conciertos

a las fuerzas y cuerpos de seguridad se consideran faltas leves y están castigadas con multas que van de los cien a los seiscientos euros

sin haber vivido ningún incidente parecido las obras de arco sobre los presos políticos catalanes

la institución ferial de madrid organismo público que acogía la muestra

en la españa contemporánea de santiago sierra en febrero de dos mil dieciocho el libro fariña estuvo más de tres meses secuestrado la jueza alejandra pontana acordó en marzo de dos mil dieciocho el secuestro cautelar del libro

gallego el joven daniel serrano de veinticuatro años fue condenado en febrero de dos mil dieciocho

como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por publicar en instagram un fotomontaje con su propia cara del cristo de la amargura popular de la semana santa de jaén willy toledo fue

de ofensa a los sentimientos religiosos a raíz de una denuncia presentada por la asociación de abogados cristianos el motivo era un post publicado en el dos mil diecisiete donde cargaba contra

tres mujeres serán juzgadas este año por participar en una performance escenificando una procesión con el coño insumiso como protagonista

fueron denunciadas por la asociación de abogados cristianos por un delito contra los sentimientos religiosos y la fiscalía pide para cada una de ellas

por un recurso de la asociación casi dos años después de los hechos y un año después de que se confirmara la sanción por vía administrativa este martes dos de abril se celebró el juicio contra el periodista de hala bedi

por grabar una intervención policial en el barrio de errekaleor aquí en gasteiz en mayo de dos mil diecisiete se trata del primer periodista sancionado con la ley mordaza por el gobierno vasco

y recientemente la discográfica el dromedario records se ha comprometido a retirar del mercado tal y como ha dicho el señor urruzuno la canción ovni de josetxu piperrak fundador y vocalista del grupo piperrak

justicia guardia civil al considerarla ofensiva

y todas estas situaciones se producen principalmente por dos vías la senda administrativa a través de la ley orgánica cuatro barra dos mil quince del treinta de marzo de protección y seguridad ciudadana la llamada ley mordaza como forma silenciosa y discreta de disuadir del ejercicio del derecho fundamental a la manifestación esto se busca mediante multas de carácter administrativo que tal y como reflejan informes de organizaciones en defensa de los derechos humanos

ya no se moviliza tanto por miedo a la imposición de multas en aplicación

es el cauce penal a través de la aplicación en determinados artículos del código penal se criminalizan conductas

cantar ciertas canciones de rap utilizar la imagen de un cristo y publicarla en redes sociales manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad

de futbol en presencia de los reyes de españa en esta última vía es en la que se aplica el código penal donde se han detectado varios problemas y es por ello que nosotras en nuestra enmienda planteábamos la modificación del código penal

y en otras ocasiones se ha aplicado un tipo penal nada definido como es el del enaltecimiento del terrorismo así como

a los llamados delitos de odio son notorias las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participaban en asambleas populares de carácter político o sindical

en la actividad política y social de nuestro país y por otro establecer un control sobre

la vida de nuestro país en los últimos años igualmente son conocidas determinadas actuaciones llevadas a cabo

actuaciones que podemos enumerar en diferentes supuestos todo este elenco de actuaciones gubernativas han tenido una clara incidencia en la restricción de derechos fundamentales

y de pensamiento derecho de reunión el derecho a la participación política y el derecho

todos ellos derechos fundamentales reconocidos por la constitución española por el convenio europeo de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles

por lo tanto hemos firmado una enmienda de transacción con el grupo eh bildu porque entendemos

que es evidente que es vulnerado de forma constante también en euskadi se trata no de prometer sino de derogar la ley mordaza y se trata también de cumplir lo que hace tres años en este mismo parlamento ustedes acordaron mila esker

gracias presidenta bien mi grupo viene a este debate a ratificar el compromiso inequívoco sin matices y sin apellidos de la libertad de expresión como una de las bases de nuestra democracia

directamente en la enmienda que presentamos con el partido nacionalista vasco sin matices y sin apellidos repito porque en el sucinto texto que nos planteaba el proponente de la moción sí que se ponían apellidos el apellido español que creemos que es lo único que explica que se haya sacado del fondo del armario una iniciativa cuyo sentido creo que nadie

que siempre lo es y más en estos tiempos en los que soplan tantos vientos que cuestionan los cimientos en los que se sustenta la democracia que disfrutamos

vientos contra la memoria de quienes sufrieron represión y también los vientos contra el derecho de toda persona a decir lo que quiera

algo que nos ha costado mucho especialmente aquí en euskadi que nos pueda alcanzar a todos

y nos ha costado incluso enterrar a muchos compañeros por defenderlo y hablo de la libertad de expresión

debatiendo sobre algo que a bildu se le quedo olvidado en un cajón allá por marzo de dos mil dieciocho así que hemos tenido que repasar

cuál era su origen cuál fue el contenido de lo que expuso el proponente

el consejero de cultura porque en teoría viene de ahí y hemos constatado cómo se ha pervertido el sentido que tienen las interpelaciones y las mociones en este parlamento

porque bildu se quejaba entonces de una supuesta censura publicitaria en etb

porque se comprobó que la decisión adoptada por el ente respondía a los criterios de publicidad aprobados por el consejo de administración cuyos miembros elegimos por unanimidad

y no se han querido cambiar porque efectivamente la publicidad ideológica no se contempla salvo para las épocas de propaganda electoral

y porque existen precedentes de limitaciones realizadas a otras instancias no necesariamente políticas por pretender difundir en cuñas publicitarias cuestiones de este tipo el señor urruzuno contaba una anécdota del señor sarrionandia en relación con el cuartel de la guardia civil en durango el señor sarrionandia decía que él

improvisaba quienes no han improvisado han sido ustedes aquí esta mañana por boca del señor arzuaga porque lo que hemos sí vistos aquí no ha sido precisamente un improvisación ha sido un acto electoral de bildu en toda regla

improvisaciones así que como quedo desmontado cualquier intento de censura en aquel momento

comisión de cultura bildu aprovechó el viaje para hacer una moción que no tenía que ver con aquello por lo que preguntaba y lo dejan en un el parlamento rechaza la censura y los ataques contra la libertad de expresión que están aplicando el gobierno español y otras instancias

qué instancias a qué instancias se refiere y a qué gobierno español el que había hace un año cuando se registró la moción el que hay ahora

cree bildu que ocurre lo mismo con un gobierno del pp que con uno del psoe o simplemente

es lo que introduce el carácter perverso del gobierno porque le puedo dar muchas muchísimas razones para hablar de censura netamente vasca de la que practicó eta y no y no queda tan atrás por desgracia si ha bildu le vale cualquier argumento para traer al presente situaciones del pasado como es esta moción de la que hoy hablamos nos permitirá que no nosotros tengamos muy presentes también el pasado muy reciente

en medios de comunicación y ser asesinados quienes tiene muy presentes haber sido perseguidos por haber hecho algo tan simple como informar y opinar

en absoluto fue el señor estarrona quien en la interpretación que da origen a esta moción

de grupos musicales se le pasó supongo que no por olvido el debate

imanol y puestos a recordar este año se cumplen treinta en el que se movilizo a toda la cultura de este país la vasca la catalana la española

para expresar también su rechazo al terror en un concierto que desbordó el velódromo de anoeta y aquello era también

pero si lo que pretende el proponente de hoy es que hablemos de otras cosas vamos a hablar y le digo la posición socialista que es muy clara

los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra el escrito

a la producción y creación literaria artística científica y técnica

a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión defendemos también que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas del país defendemos que el único límite en el respeto a los derechos fundamentales incluido el de la vida el derecho al honor a la intimidad a la propio imagen y a la protección de la juventud y de la infancia y esto supone que la libertad de expresión no puede servir de excusa para denigrar y humillar

ni para ensalzar una sola causa que justifique la aniquilación del que piensa diferente defendemos que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial defendemos que la legislación sea la garante de esas libertades

introducida por imposición de una mayoría absoluta hace cuatro años y que pretende criminalizar a quienes piensan diferentes a quien gobierna eso es lo que defendemos sin apellidos en euskadi en el resto españa y en el mundo porque no se entiende la democracia sin libertad

no se ha asumido la pluralidad que hay quienes piensan diferentes que los ha habido antes ahora y después

mucho preservarla y no será por los socialistas por quienes precisamente se va a liquidar así que sirva este debate traído de aquella manera por el proponente para que este parlamento pueda ratificarse en un compromiso inequívoco con la libertad de expresión como reflejo de una sociedad diversa

asuma que hay quienes no piensan como ellos si es lo que conseguimos bienvenido si alguien quiere promover un debate de libertad de expresión para mirar hacia fuera

para eso que no cuente con nosotros eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak ramírez escudero jauna zurea da hitza

para destacar que yo creo que hoy nuestra presidenta nos ha dado una lección de pleno uso

a la mañana se ha limitado a aplicar de forma objetiva el reglamento de la cámara y a la tarde ha

la descarga de ira que ha hecho el señor urruzuno dudo que en muchos parlamentos

hubiera aguantado lo que nuestra presidenta ha aguantado hoy y yo se lo agradezco

que este parlamento está vivo y es un parlamento libre y democrático en el cual cualquiera puede decir lo

continuamos los representantes de elkarrekin podemos y de bildu han citado

el primer punto de la moción de hoy pero yo también quería para que ustedes vean

citar otro caso este caso histórico porque en la interpelación que da motivo a la moción de hoy de hace un año y digo hace un año señor urruzuno sin tono peyorativo simplemente por poner una fecha

cuál era el qué pensaba el gobierno vasco como diciendo poniendo en duda el pensamiento del gobierno vasco respecto

y voy a contar una cosa muy breve histórica y que ocurrió en la primavera del año mil novecientos dos en la última semana de mayo de mil novecientos dos

la independencia a la isla de cuba y a sabino arana en bilbao se le ocurrió la buena idea de mandar un telegrama al presidente roosevelt para felicitarle y evidentemente entre col y col lechuga

de europa y de euskadi el texto del telegrama era el siguiente en nombre del partido nacionalista vasco

al país que presidís ejemplo de culto a la justicia de la libertad eran otros tiempos también dan vuestros estados hecho desconocido en la historia e inimitable para las potencias europeas particularmente latinas si europa le imitara también la nación vasca su pueblo más antiguo y que más siglos gozó de libertad sería libre

lo cortó y sabino arana ingresaba en la cárcel de larrinaga dos días más tarde y su único cargo era el haber intentado mandar

y evidentemente el pnv lleva ciento veinticuatro años luchando y sufriendo la ausencia

en la interpelación que dio origen a esta moción se preguntaba

de libros nos referimos generalmente al arte cuando hablamos de libertad de expresión

es un poquito retomar un breve resumen de las declaraciones que hizo

josu estarrona en marzo del pasado año decía algo así como

a ver una obra de teatro una obra de marionetas o una obra de teatro de calle o quien compra un libro

es decisión suya pensamos que ese ciudadano tiene un criterio propio suficiente y formado para entender la realidad y para analizar disfrutar rechazar aceptar

ese ciudadano adulto no necesita a nadie para rechazar una obra de arte o un libro a su nombre

y tan preocupantes como estos sucesos son muchas las restricciones que suceden en torno a la libertad de expresión

de cambios cada vez más restrictivos en el código penal o de decisiones tomadas en torno a la denominada ley mordaza parece mentira pero en este momento en españa hay más personas condenadas por hacer

y eso es preocupante por último decía creo que nuestro gobierno tiene una clara oposición ante este tema creemos que no debemos subestimar

y pensar qué actitud deben adoptar ante una obra de arte y no las autoridades o los mandatarios

hemos retirado nuestra enmienda

y vamos a apoyar el primer punto de la moción firmada por elkarrekin

asimismo el parlamento vasco renueva su compromiso de no aplicar dicha ley

que ante una ley como la ley mordaza caben tres posibilidades la primera intentar derogarla la segunda intentar cambiarla aceptarla lo que creemos que no se puede hacer es que un parlamento sobre una ley aprobada en un país democrático en unas cortes democráticas con suficiente mayoría

está en nuestra mano el cumplirla y sino derogarla o intentar cambiarla pero no creo que sea lo más normal desde el punto de vista legal que nosotros votemos

gracias señora presidenta buenas tardes a todos pues como ya les han dicho esta moción la presentan ustedes hace

de la interpelación que hicieron al consejero de cultura y en la moción la verdad es que rechazaban la censura

hoy aquí porque claro el gobierno actual es distinto

es un gobierno que ha sido gobierno gracias a ustedes entre otros ustedes lo apoyaron y es más ayer mismo apoyaron para que sacaran los decretos y entonces yo me preguntaba qué iban a poner si directamente iban a poner que a quien contra quien iba la moción era contra el partido popular

para hacer campaña para su parroquia es que está claro visto el tiempo que ha transcurrido pues yo he tenido que leer la interpelación que hizo el señor estarrona

otra cosa que no era estupefacción no solo por lo que decía él también por lo que decía

a decir lo que decían ustedes porque utilizaba un lenguaje y hacía una serie de reflexiones que solo se pueden entender en ese mundo paralelo y mezquino en el que todavía

de que yo vivía en una burbuja pero los que siguen viviendo en una burbuja son ustedes

mezquina como lo han demostrado esta mañana ustedes que siguen sin dar el paso de condenar al terrorismo que siguen se siguen negando a reconocer la dictadura a la que nos sometió eta se siguen negando siguen negando

cómo lo van a condenar si ustedes lo consideran justos siguen utilizando ese lenguaje mentiroso que tanto les gusta siguen hablando de

aquí no hay presos políticos ni presos políticos vascos ni presos políticos catalanes hay presos que incumplen la ley

y en el caso de a los que ustedes llaman presos políticos vascos son terroristas donde hay presos políticos aunque ustedes no lo quieran reconocer es en venezuela en españa no

por pertenecer a una banda terrorista a las cosas por su nombre porque ustedes siguen utilizando ese lenguaje trampa y también en esa

había habido una censura política para ser candidato que no que no era una censura política que lo que había

pues claro y las sentencias cuando gustan bien y cuando no gustan pues no

pues como les digo tenía prohibido ser candidato por una resolución judicial y también estupefacción por otra cuestión porque yo hablamos en este parlamento de censura y de libertad de expresión y lo hacemos a iniciativa de un grupo como eh bildu bien pues conviene refrescar algunas cuestiones

veintiocho de junio de mil novecientos setenta y ocho eta asesina al director jefe de la hoja del lunes

josé maría portel mayo de mil novecientos noventa y tres se distribuyen pasquines en los que se acusa a los periodistas de euskal telebista david barbero juan luis bikuña y josé maría calleja de asesinos y se les amenaza con echarles del país vasco

que obligan a la lectura de un comunicado y colocan una pancarta en el balcón de la emisora que dice caña a los perros de la pluma y el micrófono

por cuatro tiros al periodista josé luis lópez de la calle en las proximidades de su domicilio en andoain en gipuzkoa lópez de la calle era colaborador del diario el mundo quince de mayo de dos mil uno el periodista gorka landaburu sufre la amputación del dedo pulgar de una mano

en su domicilio en zarautz de un paquete bomba diez días más tarde veinticuatro de dos mil uno un etarra asesina de siete tiros al director financiero del diario vasco santiago oleaga

hay que tener cuajo cuajo para subirse a esta tribuna en este parlamento y reivindicar la libertad de expresión teniendo la mochila que tienen en sus espaldas

porque no se la quieren quitar porque siguen considerando que aquello fue justo ustedes han justificado han jaleado el asesinato y la persecución de periodistas

atentados y las decenas de amenazas contra los profesionales de los medios de comunicación y ustedes hablan de amenazas en esta tribuna de amenazas en esta tribuna

tuvieron el valor de combatirles con la palabra con la opinión solo con eso

de su libertad de prensa que les han perseguido por eso hasta la puerta de sus casas que han hostigado a sus familias pero de qué libertades de expresión están hablando ustedes

defienden ustedes la suya que se diga lo que ustedes quieran porque si no cartas bomba o pintadas contra los periodistas esa es su libertad de expresión y ustedes hablan de libertad y de democracia que no que hoy lo han demostrado aquí

muy grande muy grande porque ustedes siguen sin condenar

todos todos los derechos fundamentales el derecho a la vida el derecho a pensar como cada uno quiera a expresarse con libertad a vivir en libertad

que se hayan pisoteado es más siguen jaleando siguen recibiendo como héroes como merecedores de homenajes aquellos cuyo único mérito ha sido el asesinato la extorsión el secuestro la pertenencia a una banda terrorista a una banda terrorista

y eso es enaltecimiento del terrorismo y por eso nosotros no estamos a favor de que desaparezca el artículo quinientos setenta y ocho del código penal nosotros

ustedes hablan de democracia cuando su proyecto político

y la discrepancia se castigaba con dos tiros en la nuca con bombas lapa con cartas bombas o con el señalamiento público pero es que es más a día de hoy a día de hoy si un estudiante en ejercicio de su libertad de expresión

se le da una paliza se le da una paliza y a quien coloca una bandera de españa en un balcón en cuadrilla se va a señalarle y a insultarle

a ustedes como les digo le falta mucho mucho trecho por recorrer

lo primero que hay que hacer es respetar la ley y a ustedes la ley se las trae al pairo al pairo

ustedes han colocado los lazos amarillos y anda que para quitarlos no ha habido que hacer

pero como les decía hay que cumplir la ley y

sabe que está incumpliendo la ley y ese incumplimiento tiene consecuencias legales como ustedes como ustedes que lo han hecho a propósito como ha sido en su caso la admisión

por parte del tribunal superior de justicia de cataluña de la querella de la fiscalía por desobediencia

que eso es un desafío al estado de derecho y hacer gala de ello y hacer gala de ello poniendo un tuit que se está incumpliendo la ley eso es lo que hizo el señor torra y me imagino que ustedes

amarillos siguen ustedes con un lenguaje falaz con un

porque en cataluña a los que se denominan españolistas los señalan les cubren con sus fotografías las fachadas les marcan sus domicilios con diana

y aquí ya les he dado ejemplos porque ustedes como les digo tienen un doble rasero y hablando de doble rasero pues en podemos también son maestros

cuando les hacen a ustedes una ofensa pero ustedes aplauden las ofensas que hacen

a los demás ustedes presentan una proposición de ley que es la que traen hoy aquí de modificación del código penal con relación a la modificación de los delitos relativos a la libertad de expresión y además hacían en la exposición de motivos de esa proposición una definición apocalíptica de cómo

es que en españa no se respetan las libertades que es una democracia de bajo nivel y que por lo tanto

pero mire los tribunales son los que definen lo que es delito y lo que no lo es y españa

ninguna ninguna porque en españa la libertad de expresión está consagrada en la constitución está regulada por las leyes y garantizada por los tribunales igual que en irán verdad señores de podemos igual que en venezuela igual igual está regulada

en españa miren aquí parece como que si uno no dice hace una proclama de respeto la libertad de expresión no la respeta yo respeto la libertad de expresión

pero yo creo que desde los dieciocho o los veinte la llevo respetando y precisamente

precisamente porque quería que todo el mundo tuviera derecho a poder ejercitar su libertad de expresión que aquí el que se sintiese vasco y español pudiese decirlo perfectamente sin necesidad de que nadie le señalara

un tiro en la nuca por eso porque mire la libertad de expresión

ni el insulto contra las personas o los grupos que es lo que se ha hecho hoy aquí esta mañana

para humillar para incitar al odio tal y como dice la jurisprudencia española vasca y europea eso puede ser un delito

son los tribunales son sus resoluciones porque en democracia

es el respeto el respeto a los demás y el respeto a la ley y a las decisiones judiciales pero siempre siempre señores de podemos no un día sí

está en la diferencia entre quienes tienen hoy en día el poder de recordar lo que pasó y lo que no

abesten da aitor zabaleta oé alguien se imagina si en san mamés en ipurua en anoeta en el sadar

lo mismo con otro nombre que no lo voy a poner hori da hemen gertatzen ari dena orduan

del dos mil dieciséis desde cuando defendiste en comisión el segundo punto que dices hoy que no lo puedes votar qué ha cambiado

las seis mil ochocientos actuaciones de la ertzaintza es eso necesitáis más luz verde a la ertzaintza para que siga aplicando la

a miembros del movimiento feminista hori da behar duzuena

pero claro franquistas terroristas eta dictadura bolivariana venezuela

ya hemos utilizado todos los términos que ayudan a que cualquier debate se convierta en un toma y daca

y lo entiendo que estamos en precampaña pero ahora si dejamos a un lado la función de las cuatro y nos centramos en la propuesta

antes de ello es verdad voy a empezar señora llanos de verdad yo creo que usted ha salido aquí

venezuela irán irán venezuela y le diré que ningún problema porque esta mañana mi compañero ha estado hablando de venezuela y de irán quizá me puede usted contar algo por sus socios de vox en andalucía y me puede iluminar

pues ahí se quedan con el barro porque creo que es suficientemente importante la libertad de expresión y claro que no nos hemos centrado en el estado además es que creo que no le he entendido o creo que usted no me ha entendido claro que nos hemos centrado en el estado español es que existe falta de libertad de expresión a veces

es que no me preocupa la libertad de expresión si me favorece o no me favorece lo que me gusta o lo que no me gusta lo que cuadra con mi ideología o no que no que es que es un derecho es que

que dice cosas que no me gustan o que me parecen barbaridades tengan el derecho a decirlas y eso de lo que estamos hablando hoy de absolutamente nada más y señor

pues la verdad es que lamento que ustedes no vayan

del segundo punto porque es verdad que hace tres años en esta misma cámara se llega a un acuerdo y lo que no me queda claro es si ahora acordamos el punto uno tal y como ustedes han hablado de que están a favor de votarlo si luego dentro de dos tres años no vamos a tenerlo en cuenta

son para cumplirlos y hay una serie de evidencias sobre las multas y sanciones que tienen que ver con la ley mordaza que se aplican en euskadi cuando textualmente

de dos mil dieciséis que se adopta el compromiso de que no se aplique

y habrá que ratificarlo tres años después es una cuestión entiendo yo de coherencia nosotras en definitiva lo tenemos muy claro entendemos que quizá no es el día más adecuado porque ustedes han venido hoy a ganar votos pero

no se puede en absoluto jugar no se puede caer

llegar a acuerdos y entender que la libertad de expresión es una cosa que nos compete a todas mila esker

no era mi intención ni siquiera usar el segundo turno pero en fin

más remedio en fin yo no le he dicho ninguna mentira cuando he hablado que aquí no hace mucho tiempo

coartado en este país para decir lo que quería porque tenía miedo de que fuera amenazado perseguido secuestrado o incluso asesinado como pasó con muchos compañeros nuestros

porque no traía una causa reconocible respecto lo que se usaba como motivo de la misma se ha usado después

corresponde a lo que usted finalmente ha dicho en la tribuna o hubiera dicho otra cosa tengo serias dudas pero en fin

que no se pueden acordar de aquellas cosas porque ya no están entre nosotros y no les he oído nunca a ustedes decir que aquello fue injusto

ustedes respecto a lo que hizo eta todavía están por dar ese paso y es muy triste

muy triste tener que reconocerlo y creo que ustedes lo saben perfectamente

en la retina de cuando asesinaron a nuestro compañero isaías carrasco

ofreció guardar un minuto de silencio por el señor carrasco duró exactamente

el tiempo necesario para que toda su gente la que ustedes controlan en ese mundo

para que ni siquiera se pudiera guardar un minuto de silencio por un concejal asesinado del partido socialista

en esta tierra por lo tanto en fin lecciones muy poquitas de su parte

simplemente para decir que lamento mucho pero la señora garcía sabe que hemos estado a punto de llegar a un acuerdo

en la que se recogía nuestra enmienda y prácticamente la integridad de la suya pero ustedes han preferido pactar con bildu

un punto dos en el que se pide que este parlamento apruebe que se incumple la ley no lo podía aceptar yo no le veo a la señora consejera de seguridad

ni yo ni nadie pero bueno usted no lo critico usted ha preferido pactar con bildu

yo no la critico pero en fin a lo mejor hay algo de en fin actuación subsidiaria respecto de bildu en este parlamento por parte de ustedes

hablando del motivo principal del debate que era cierta carencia de libertad de expresión y las medidas a adoptar para solucionarlo pues acabamos sacando el pasado y en este parlamento y en este país

y es muy difícil que el pasado no nos nuble el presente y nos deje una especie como de bruma en el futuro decir que me parece que el artículo que el primer punto de la moción que aprobamos hoy es un muy interesante hablando de presente y hablando de futuro sin mentar el pasado que parece que es lo que cambia todo en este parlamento y creo que también es

una evidente falta de libertad de expresión

acuerdo de hoy en lugar de presentarlo bildu lo presenta podemos y que usted no tiene toda esa capacidad

pensar en qué es lo que vamos a aprobar y fijarnos menos en quién es el que lo ha presentado porque si fijamos

ustedes nunca votan nada aunque últimamente evidentemente están siendo muy buenos compañeros de voto de ellos

dejemos de pensar en quién es el autor de la propuesta porque entonces acabaremos como hoy tirándonos los trastos

al margen de quién la haya hecho el parlamento vasco defiende y protege los derechos fundamentales y rechaza todo tipo de censura

que se lleva a cabo desde cualquier institución pública por tanto el parlamento vasco insta al gobierno español a modificar el código penal y a derogar la ley cuatro barra dos mil quince de seguridad ciudadana para proteger la libertad de expresión

es un acuerdo que viene bien para todo el mundo que era necesario y creo que deberíamos eso dejar de mirar al pasado con ira porque si no
puede que no lleguemos a arreglar los problemas del presente besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez

no señor ramírez escudero no se trata de quién lo proponga que también que luego iré con ellos porque

pues está más legitimado o no para hablar de determinadas cuestiones mire

no les iba a decir nada pero bueno lo que dijo el señor consejero

es de nota porque sobre cómo se ejercita la libertad de prensa libertad de expresión y el respeto al que piensa diferente en etb también hay mucho

a traer aquí a ese programa de etb pagado con el dinero de todos los vascos de los que solo se sienten vascos y de los que nos sentimos vascos y españoles y en el que directamente se nos insultaba

y se nos ponía como se nos ponía verdad es que la libertad de expresión para algunos es insultar

al diferente y eso no es libertad de expresión y ustedes señores de podemos señora garcía yo de la dictadura bolivariana a ver si me escucha no he hablado ahora de venezuela son ustedes defensores un rato pero es que ustedes dicen

lo suyo que su prensa es la prensa vetada los medios manipulados los jueces y fiscales adictos al gobierno del cambio y al que no

si ustedes son expertos en el doble rasero si ante un poema de irene montero

qué hizo la señora irene montero pues poner una demanda y pedirle setenta mil euros al que había hecho ese poema pero no se trata de poder decir lo que uno quiere no eso sí

y no sé si me va a venir aquí a decir algo su pareja dijo que azotaría a una presentadora no sé la señora arana que opinará de eso si eso es defensa de la libertad de expresión o qué es defienden la libertad de expresión de quien ofende a las víctimas del terrorismo
de quien se mofa de irene villa mesedez isiltasuna entzun mesedez irene montero aplaude aplaude a una humorista

porque los chistes te pueden gustar más o menos pero el humor no es delito

y considera que se debe suspender la obra hay que defender la libertad de expresión

por apoyar el federalismo frente al independentismo llamó

ha definido a españa como el mayor prostíbulo del mundo y al estado español como un grupo terrorista todo eso es ejercicio de la libertad de expresión ahora eso sí eso sí

de viaje con nosotros cometieron la osadía de meterse con jordi puyol aquello se consideró que era un ataque a cataluña

y no me haga usted aspavientos porque si usted hubiera estado en esa época hubiera estado vamos haciendo

porque todo es ejercicio de la libertad de expresión y me reitero monográfico de eta

son ustedes porque siguen en la misma y no cambio ni un ápice de lo que he dicho antes y traía a colación antes de lo de esta mañana pero es que ahora viene más a colación ustedes no tienen ninguna legitimidad ninguna ninguna

lo siguen siendo porque ustedes es lo que han defendido y lo que han representado lo siguen siendo el asesinato la amenaza la persecución de periodistas de todos aquellos que en ejercicio de su libertad de expresión decían lo que a ustedes no les gustaba y todos eso ataques que ustedes hoy todavía los consideran justos

sube aquí y dice verdaderamente fue injusto todo el mundo tiene derecho a su libertad de expresión pero no no lo sigue considerando

mucha cara dura para venir hoy aquí y no ejercitar la libertad de expresión insultar a la que estaba arriba que no había dicho nada insultar a quien estaba arriba mucha cara dura y ustedes decir

lo que he relatado yo aquí antes es una muestra de su macabra manera de entender la libertad de expresión y ustedes dicen que no hay que hablar del pasado claro que hay que hablar del pasado

como sucedió no esa visión edulcorada que ustedes quieren hacer que hoy la han conseguido mire tengo que darles la razón

de la ley de esta mañana porque aunque para algunos tuviese un objetivo que nosotros podemos compartir que es redactar las víctimas para ustedes no y es lo que han conseguido que es dar carta de naturaleza a la teoría del conflicto directamente lo ha dicho el portavoz de bildu

esta ley supone contar lo que pasó las múltiples violencias eso es

por qué porque son los socios los socios para hacerlos presidente y los socios aprobar los decretos para mantener el falcon y el sillón de la moncloa

ustedes que han sufrido lo que han sufrido igual que nosotros deberían decirle al señor sánchez
que hay cosas que no debían admitirse ni para mantener el falcon eskerrik asko llanos anderea

delako primero en primer lugar sí que tenemos

que la iniciativa presentada por el grupo de elkarrekin podemos es un tanto extemporánea porque por una parte se presentó

de todos los jueves ordinarias pero sí que es cierto que esta iniciativa señor bollain se presentó

parece que ustedes no tenían o no hasta el momento no han tenido mucha

hasta casi dos años después un tema absolutamente prioritario para debatir en esta cámara porque en el ejercicio de esa potestad que corresponde a todos los grupos pues ustedes hasta esta fecha

este tema para incluirlo en el orden del día hasta como digo casi dos años después y por otra parte decía lo de extemporáneo o fuera de lugar si se me permite señor bollain y con todos los respetos este comentario

una proposición de ley sobre este aspecto que además se ha finalizado

están claramente fijadas en todas las enmiendas que hemos presentado los diferentes

gaur egungo egoera ikusita ondoren que la política lingüística requiere un cambio

reconocida en los últimos estudios efectivamente nosotros hemos afirmado en numerosas

de esta cuestión que los distintos estudios ponen de manifiesto claramente que aumenta el conocimiento del euskera pero no su uso

iritzia el informe del consejo vasco de educación claramente dice que el euskera ha descendido en el ámbito doméstico

hablan en euskera también hemos conocido y esto motivó una pregunta de mi compañero ruiz de arbulo en relación a la utilización del servicio zuzenean que como ustedes todos saben es el servicio

del gobierno vasco y claramente en las cifras hablan por sí mismas las cifras dicen claramente que

atenciones que se han proporcionado por el servicio de zuzenean

como se pone de manifiesto y aparece en la nota de prensa y en los datos que ha proporcionado el gobierno el número de

y el número de consultas que se hacen en euskera es el doce coma nueve por ciento es decir los ciudadanos vascos podemos dirigirnos a la administración tanto en euskera como en castellano pero los datos ponen de manifiesto que mayoritariamente la sociedad vasca cuando se

a través de este servicio lo hace mayoritariamente en castellano pero eso no quiere decir no me den la vuelta a la situación que no se garantiza

sí pero como ese derecho existe las personas los ciudadanos vascos cuando nos dirigimos a la administración

y aquellos que queremos hacerlo en euskera tenemos la posibilidad de hacerlo en euskera por lo tanto la posibilidad de dirigirse a la administración y de ejercer el derecho en hablar en euskera ante la administración

de otra forma otra cosa es que algunos les gustaría que esas cifras fuesen distintas pero la realidad obviamente de los hechos es la que es y miren es que además si comparamos los datos del dos mil diecisiete con los del dos mil dieciocho las peticiones

casi un punto y medio por lo tanto la tendencia parece ser que es a la baja desde la absoluta libertad que de cada persona ejerce cuando se dirige a la administración

euskara ikasten du por eso creo que es conveniente que nuevamente nos hagamos la reflexión

su uso aumenta el conocimiento pero no aumenta su uso y por qué

a un euskaltegi aprende euskera porque quiere aprender euskera o realmente

porque luego a la hora por ejemplo de acceder a un empleo público pues

se puntúa de una determinada manera como claramente todos conocemos que sucede en la administración vasca

por lo tanto como decía todo el mundo tiene el derecho a relacionarse en euskera

berrikusi behar dugula porque los resultados desde luego después

los ingentes esfuerzos económicos y personales porque aquí hay muchos esfuerzos personales que se hacen para aprender euskera

la motivación de aprender euskera y eso es lo que tenemos que conseguir cambiar y eso es lo que tiene que conseguir cambiar las políticas lingüísticas que igual hay que darle una vuelta a esas políticas impositivas

vaya a aprender euskera porque tiene que acreditar un determinado perfil a la hora de acceder a un empleo público

diaria como decía entendemos que hay una iniciativa ya en tramitación los distintos grupos hemos tenido posibilidad de presentar las correspondientes enmiendas nosotros consideramos absolutamente

se habla del debate lingüístico de la política lingüística que para nosotros obviamente es manifiestamente mejorable a los resultados nos remitimos y sobre todo teniendo en cuenta que creemos que el camino no es la imposición

de aquella persona que se dirige a la administración o la libertad de elección de aquellos padres que quieren que sus hijos estudien en todo el modelo quinientos o también la libertad de elección de aquellos padres que también quieren que sus hijos en el modelo a que como todos sabemos en esta comunidad autónoma no está del todo o absolutamente garantizada por eso digo que presentamos una enmienda de totalidad porque creemos firmemente en que hay avanzar en el impulso del euskera en esta comunidad autónoma

el principio de no discriminación y desde luego dejando al margen definitivamente ya de una vez por todas esas políticas impositivas que están consiguiendo precisamente

contrario al deseado por ello nosotros vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad creo que es una enmienda razonable y no nos opondremos

en la enmienda de transacción acordada por todas estas razones en las que acabo de incidir y que luego en el turno de réplica

de las réplicas concretas que se produzcan de los distintos grupos

sin garantizar el aprendizaje gratuito para toda la población no existe y por eso creo que debemos

nuestro tesoro nuestro idioma para hacer política entre nosotros y creo que hay que remar conjuntamente para llegar a buen puerto eskerrik asko eskerrik asko

las consultas en castellano en la diputación foral de álava en castellano doscientos diez mil novecientos setenta y dos

usted cree que en la diputación foral de álava precisamente el territorio

conocimiento y uso del euskera se hace de los tres territorios no está garantizado el uso del euskera usted cree

consultas que se realizan en euskera no se han podido realizar en euskera ahí están los datos

y mil diecisiete en euskera obviamente creo que en la diputación foral de álava está absolutamente garantizado y con creces el derecho

cuestión es que los ciudadanos vasco desde nuestra libertad

a la administración lo hagamos unas veces en euskera u otras en castellano desde nuestra absoluta

mire no estamos de acuerdo con las medidas impositivas es que creemos que además han conseguido el efecto no estamos de acuerdo con medidas como la última que va a llevar a que se reserve un cuarenta de las plazas

es que no estamos de acuerdo con medidas absolutamente discriminatorias para una parte de la ciudadanía vasca aquellos ciudadanos vascos que no saben euskera que además no tienen el deber de saber euskera tienen el derecho a saber euskera pero no el deber a saber euskera por lo tanto no estamos de acuerdo con estas medidas absolutamente discriminatorias como no estamos

de forma absolutamente desproporcionada en relación a otros méritos por ejemplo para ser médico en esta comunidad autónoma y luego que gracias a esos méritos se le puntúe mucho a esa persona los méritos pueda elegir un destino

eligen los consultorios de vitoria bilbao y san sebastián y no

hay una demanda de atención en euskera o acaso aquí

por parte de la administración porque no puede ser de otra forma y no vamos a cuestionar esto porque sería demás cuestionarnos

fundamental en este momento que no vendría absolutamente nada a cuento y estaría absolutamente fuera de lugar o no tienen los padres

del modelo lingüístico en el que quieren que estudien sus hijos está absolutamente garantizado en esta comunidad autónoma

está absolutamente garantizado en esta comunidad autónoma que los padres que quieren elegir para sus hijos el modelo a está garantizado ez ez dago ez dago bermatuta

mire yo no sé qué me pasa últimamente con la redacción de algunas

cómo que no está en la agenda política del gobierno vasco la política lingüística

prioridad es que la política lingüística y el euskera yo no he detectado que sea un problema que venga en los sucesivos euskobarómetros que se hacen en esta comunidad autónoma no aparece entre las principales preocupaciones de los vascos sí aparece el paro sí aparece la economía sí aparecen otras preocupaciones

pero acaso no se respetan los derechos lingüísticos en esta comunidad autónoma desde luego

quieren dirigirse a la administración en euskera absolutamente miren las cifras en la diputación foral de álava eso sí la

es absolutamente muy pequeña en relación comparativamente

de los derechos de muchas personas que no saben euskera pues yo creo que no y en ese sentido

porque no se garantizan los derechos de aquellos que quieren elegir el modelo a para sus hijos aquellos que quieren acceder a una administración y que puedan acceder

en la administración teniendo como objetivo la igualdad entre los ciudadanos sí claro

en relación a otros méritos bueno en definitiva uste dugu gainera